como agente importante y vamos a invertir diecisiete millónes de euros actuando sobre treinta y cinco de los cuarenta edificios propiedad de los parques para abordar la implantación inteligente de placas solares y gestión de la energía de tal manera que también aportemos en ese sentido

y en el último eje de impactar en el servicio a las empresas pondremos en marcha bajo la marca

servicios a los profesionales que trabajan allí vinculados al deporte a la conciliación laboral a la movilidad interna otro tipo de servicios k business para generar espacios de desarrollo de negocio

atraer talento para impulsar nuevos mercados y desde luego para adaptarnos tecnológicamente a lo que está ocurriendo en estos momentos eskerrik asko

es que estamos muy lejos de donde deberíamos estar y según naciones unidas con los compromisos actuales las emisiones incluso aumentarán

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la unión europea ha sido de un veinticuatro por ciento y nuestra

ha sido del once por ciento muy lejos de la senda europea y lo peor es que el único período en el que hemos tenido reducciones significativas ha sido entre dos mil ocho dos mil doce en la gran recesión

falta tratar la emergencia climática como lo que es el mayor reto colectivo al que nos enfrentamos como sociedad y por concretar el reto sincronizar nuestro camino con los objetivos europeos es decir llegar a dos mil treinta con un cincuenta y cinco por ciento menos de emisiones que en mil novecientos noventa supone para nosotros y nosotras

a la mitad la mitad de lo que emitimos hoy en nueve años

en los que el ritmo de reducciones ha sido de cero coma uno por ciento al año yo le pregunto por sus políticas no por el histórico de euskadi espero que quede clara la magnitud del problema

yo también le voy a ofrecer algunos datos señor otero estamos comprometidos con retos ambiciosos estas son nuestras acciones por el clima primera comunidad en aprobar

proyecto de ley de transición energética y cambio climático en elaboración para alcanzar la neutralidad climática en dos mil cincuenta

al impulso del transporte sostenible y a la utilización de energías limpias

como proyecto de colaboración público privada las inversiones

y no es maquillaje contable señor otero alcanzaron los quinientos sesenta y siete millónes de euros el ochenta por ciento para proyectos de eficiencia energética estamos ejecutando el proyecto life urban klima dos mil cincuenta cofinanciado por la comisión europea

contamos con el proyecto ekiola para la promoción de cooperativas ciudadanas de generación de energía sostenible y euskadi se ha sumado en la cop veintiseis de glasgow a la alianza industrial mundial para alcanzar

el gobierno vasco está liderando esta apuesta y así lo reconoce la sociedad vasca estamos comprometidos con la acción por el clima y ya que me imputan ustedes el éxito o el fracaso de algo que ha de comprometer a toda la sociedad yo estoy dispuesto y agradeceré que ustedes dado que parece que no les importa lo que está sucediendo con el gas

moduari buruz rico jauna zurea da hitza gracias señora presidenta buenos días a todos y a todas señora vicelehendakari el pasado

las principales líneas presupuestarias del departamento de trabajo y empleo un proyecto de presupuestos en el que actualizamos la apuesta que se ha hecho desde el principio por su departamento de seguir haciendo frente a lo urgente sí pero sentando

la necesaria transformación de nuestro sistema de empleo y de inclusión donde también se inserta el proyecto de transformación de lanbide lanbide hobetzen con este proyecto de presupuestos actualizamos la hoja de ruta marcada por el departamento sobre las mismas bases de prudencia de confianza pero también de rigor ese mismo

pero es el mismo rigor que nos lleva a no detenernos ni medio minuto en la autosatisfacción sino a seguir centrados en los retos que tenemos por delante y que además se recogen en la estrategia vasca de empleo dos mil treinta que usted nos trajo a este parlamento para recibir las aportaciones de todos los grupos como así fue

de ruta y además estamos convencidos de que con estos presupuestos para el año dos mil veintidós vamos a conseguir los objetivos marcados

en inclusión y en igualdad a la que se suma a la d del diálogo social que para los socialistas es tan importante y señora vicelehendakari en ese contexto usted nos planteó proyectos novedosos que van a exigir un nuevo esfuerzo de lanbide para conseguir ese objetivo final que todos compartimos de un servicio público eficaz y eficiente y lo hace en un momento en el que lanbide ya está sumido en un profundo transformación estamos absolutamente convencidos de que ustedes tienen perfectamente marcada la hoja de ruta y por eso le queremos preguntar cómo se va a compaginar estos proyectos novedosos

que ahora mismo este mes de noviembre cumple diez años desde que asumimos en euskadi las políticas activas de empleo y en esta década ha tenido que organizarse mientras intentaba atender la salida a la crisis de entonces y después ha tenido que afrontar otra crisis totalmente distinta donde no se han dejado de atender

pero no nos conformamos con la gestión queremos convertirlo en un servicio de confianza al que recurran las empresas que buscan personal cualificado y al que acudan las personas

estamos cambiando la forma de trabajar con personal que se implica en los proyectos que se forma para orientar a otros con una nueva oficina que será virtual

por la web con un nuevo diseño también de las propias oficinas físicas

acudiendo de forma presencial pero necesitan acceder por vías distintas porque sus necesidades son distintas y el contenido de ese proyecto transformador lo hacemos también con programas

no basta con contar con las mejores oficinas si no hay confianza por parte de quienes contratan por eso lanzamos una nueva unidad de empresas para salir a buscar a quienes generan empleo no basta con gestionar líneas de ayudas para jóvenes creamos

mueven con mucha soltura para poder interrelacionarse entre ellos y volver a ser capaces

talento a euskadi no es suficiente con incluir la perspectiva de género en los programas que hacemos hacen falta acciones concretas dirigidas en exclusiva a las mujeres para que se atrevan a entrar en los oficios más masculinizados

el proyecto morrokotudak no es suficiente con crear una línea específica para mayores de cuarenta y cinco años hay que ofrecerles vías claras y ahí están aukera berri

todo esto y mucho más es lanbide hobetzen no es una visión parcelada es una visión conjunta de cómo guiar a este servicio público hacia la eficiencia y hacia las demandas que euskadi necesita en este siglo veintiuno es lo que aprobamos ayer en el consejo de administración de lanbide con todos los agentes sociales

lehendakari jauna el pasado viernes usted dio un discurso en el marco del fórum europa durante más de una hora usted se

de euskadi en un tiempo que calificó de oportunidad a nuestro grupo le resultaron especialmente llamativas entre otras cuestiones sus referencias a su proyecto de presupuestos al que calificó como punto de inflexión el marco

perfectamente en nuestro grupo y es similar al de este año centrado principalmente en el equilibrio presupuestario ha costado una inversión pública ridícula plantillas públicas menguantes y privatización de servicios y bienes producidos por el sector público ustedes hablan de cambio de paradigma de punto de inflexión y sin embargo plantean un crecimiento de la inversión que a duras penas recupera

previo a la crisis del año dos mil ocho dónde está ese cambio de paradigma aurreko urteetako logika berari jarraitzen dioten aurrekontuak ez dago aldaketarik el presupuesto del año uno tras el gran shock de la pandemia

por eso le preguntamos dónde está el punto de inflexión eskerrik asko hernández jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

contribuir a un punto de inflexión en el proyecto de presupuestos presentado

de presupuesto casi ocho de cada diez casi ocho de cada diez euros a políticas sociales

lehendakari jauna un punto de inflexión requiere de cambios no solo de cifras

en relación a las políticas que han regido la política económica durante la última década políticas impuestas voy a decir de forma violenta y antidemocrática como vimos en grecia con gran crudeza y es cierto que ustedes han anunciado que lo van a aprovechar pero en lo visto hasta ahora no hay cambio en las políticas de este gobierno y no hay cambio en estos presupuestos en lo relativo al déficit ustedes no han querido hacer una política realmente contracíclica que apueste decididamente por un liderazgo de lo público para salir del mayor shock económico de la historia reciente nosotros le hacemos una invitación sabe usted que hemos ido a negociar los presupuestos con su consejero de economía

humilde amplíen ustedes la tasa de referencia y agoten los límites de endeudamiento

invirtiendo en lo público qué mensaje lanza el gobierno a la sociedad cuando se va a dejar en la calle a cuatro mil trabajadoras y trabajadores que han luchado en primerísima línea contra la pandemia nuestro espacio político ha peleado

y solo lo ha conseguido en parte pero esto es una oportunidad que ustedes deberían aprovechar y que no están aprovechando también hubiera supuesto un punto de inflexión muy importante hacer una apuesta decidida por la educación pública tras décadas de conciertos y de políticas educativas excluyentes lanzando

a todas las trabajadoras de la red pública que son prioritarias sobre la provisión de bienes públicos más allá de las entelequias tecnológicas prometidas no se pueden comprometer inversiones en la producción de bienes y servicios de carácter económico

la creación de una empresa pública de energía inversiones que disciplinen al capital más especulativo y que envíen un mensaje claro a la ciudadanía es posible y deseable proveer bienes y servicios desde estructuras cien por ciento públicas y con vocación de servicio público y no de beneficios

puestos de trabajo nosotros señor urkullu

la mano de cara a estos presupuestos pero para cambiar de paradigma no para mover unos números

para eso entendemos que hace falta voluntad política un punto de inflexión necesita de autocrítica pero sobre todo de cambio nosotros no vemos
en estos momentos ese cambio en estos presupuestos eskerrik asko hernández jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor hernández es su punto de inflexión en todo caso yo insisto

llegando al límite con un compromiso de que cuando se restablezca el equilibrio presupuestario el objetivo de déficit y el límite en el

no dejemos a otras generaciones lo que nosotros hayamos generado

empresa pública de energía ente vasco de energía shesa pacto social de un nuevo modelo educativo estamos debatiendo sobre lo que es hizkuntza hitzarmena y la posibilidad de una nueva ley de educación

reforma del sistema de garantía de ingresos estamos en ello señor hernández y lo sabe usted perfectamente

plantean ustedes además enmiendas valoradas en quinientos millónes de euros y representa el total

desde el principio de respeto al ámbito de competencias y desde el respeto también al principio de realismo no sé si es realismo lo que ustedes plantean sinceramente

porque va a contribuir el relanzamiento económico la generación de oportunidades de empleo y el fortalecimiento del modelo vasco de protección social y porque va a ayudar a avanzar en las tres transformarlas globales energía

demográfica sanitaria y social algunas de sus propuestas responden a estos objetivos de carácter presupuestario nuestra disposición es dialogar y acordar

el proyecto de presupuestos presentado en esta cámara va a ser la herramienta principal para el relanzamiento económico y social de euskadi en dos mil veintidós y supondrá un punto de inflexión

todos los recursos excepcionales del plan especial covid para salud educación y protección social se mantienen de cara al año que viene contamos en términos absolutos y relativos con más recursos que nunca para gasto social y hemos incrementado como lo he dicho un cincuenta por ciento la inversión

el proyecto de presupuestos es una herramienta para impulsar el punto de inflexión pero contamos con más instrumentos aprobados

el programa euskadi next la agenda dos mil treinta el plan de internacionalización

programa de transición energética y economía circular o el plan de digitalización

acelerar el proceso de reactivación más empleo contribuiremos a generar dispondremos de más recursos y en definitiva más aportaremos a la cohesión y al equilibrio social

esta semana ha acusado usted a la comunidad de madrid practicar el dumping fiscal

de su socio sánchez ahora que no tendremos ave hasta dos mil veintisiete y encima sin entrar

comprendo que prefiera usted que se hable de otra cosa o tal vez lo que de verdad le molesta es que la señora ayuso haga lo que ustedes no hacen

y reducir la presión fiscal sobre los madrileños ayudando a impulsar la salida de la crisis porque no tiene sentido que aquí en el país vasco los impuestos sean más altos que en madrid y que nuestros tipos de irpf lehendakari sean más altos

es increíble que proteste usted cuando otros ejercen sus escasas competencias en materia fiscal

aquí sea incapaz de impulsar junto a las diputaciones forales la imprescindible reforma fiscal el concierto no puede ser decorativo y eso es lo que parece si

sin concierto sin concierto los ciudadanos las familias los autónomos y nuestros autónomos y empresarios aquí en euskadi anhelan lehendakari anhelan las condiciones económicas y fiscales de madrid por lo tanto menos criticar

y más acuerdos entre las instituciones vascas para poner el concierto al servicio de la recuperación económica y el empleo no es tan difícil lo hicimos en el pasado lehendakari

lo recordará presumía de bajar impuestos y recaudar más y suprimíamos el impuesto de sucesiones para que los vascos no se fueran a madrid

isiltasuna mesedez suprimíamos el impuesto de sucesiones para que los vascos no se fueran a madrid

y cuando otros lo hacen y ejercen sus competencias con éxito parece que a ustedes les molesta incumplió usted los acuerdos con el pp

yo se lo vengo planteando en nombre de mi grupo desde la misma sesión de investidura pero usted hace lo contrario y en la ley de presupuestos nuevas subidas fiscales

absorbiendo cada vez más y más recursos vaciando las arcas forales

es lamentable se lo tengo que decir pero se parece usted cada vez más a esos nacionalistas catalanes para lo malo

del gobierno de la comunidad de madrid para mal de los vascos tan golpeados por la pandemia yo creo que tiene que imitar lo bueno

haga memoria de lo que hicimos antes repita los aciertos propios en vez de criticar los aciertos ajenos por eso le pregunto está dispuesto

junto a las diputaciones una reforma fiscal que rebaje impuestos eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

les gusta el modelo de madrid y a los empresarios vascos también también

los empresarios vascos defienden el mayor atractivo fiscal de madrid a euskadi usted califica de dumping a madrid y cómo

lo suyo es abuso fiscal castigo fiscal aquí

está diciendo que las políticas de la señora ayuso para euskadi

que nos estamos quedando atrás las cifras y los hechos cantan por eso los empresarios le han sacado a usted los colores sin ir más lejos hasta piqué el capitán del fútbol club barcelona dice

sin duda alguna mejoraría señor urkullu en hacerle caso y evitar polémicas en las que sale trasquilado

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz respeto opiniones de representantes empresariales desde sus propios intereses

y nuestro objetivo es ayudar a conseguir el mejor nivel de vida posible en una sociedad cohesionada la fiscalidad es una herramienta no es un fin en sí mismo defendemos una fiscalidad progresiva y equitativa que contribuya a obtener recursos para redistribuirlos a través de las políticas sociales

no he sido el primero en utilizar el calificativo de dumping fiscal ya que su intervención está plagada de referencias a lo que han escrito determinados prescriptores de opinión

repase también las acusaciones que hemos sufrido en euskadi acusaciones y denuncias por alguna comunidad autónoma como la relativa a las vacaciones fiscales

constato una diferencia con su modelo el partido popular defiende un modelo neoliberal que no compartimos defendemos

para garantizar las políticas sociales en línea con los modelos europeos más avanzados aquellos que nos critican por neoliberales creo que hoy tienen una buena prueba de lo que es su falacia reducir de forma general los impuestos es limitar la cohesión social

el equilibrio y la cohesión social es un objetivo de país debemos contar con los recursos necesarios para que las políticas públicas sean suficientes y sostenibles

sin utilizar descalificaciones como las que desgraciadamente hemos tenido que escuchar

especialmente de madrid calificando el concierto económico vasco como privilegio insolidario o las acusaciones injustas que he escuchado en las conferencias de presidentes tanto en san millán como en salamanca precisamente por defender tanto la como el acuerdo necesario en cumplimiento del concierto

de riesgo unilateral y de armonización fiscal con el resto del estado y también con europa planteamos una política fiscal común que no uniforme

reforzando el compromiso en la lucha contra los paraísos fiscales y el fraude defiendo un modelo social que es posible gracias a la gestión de nuestros propios recursos

que en defender el modelo de euskadi usted reivindica autonomía para las decisiones de madrid

por mi parte me dedicaré a defender la autonomía y respeto para las decisiones de euskadi

lo que nos corresponde y miraremos a los países avanzados de europa la valoración del efecto madrid la dejo para las autonomías de régimen común

gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías buenos días a todos trescientos setenta y ocho crímenes sin resolver

trescientos setenta y ocho asesinatos que no han sido juzgados ni tienen sentencia firme

una misión europea se desplazó hasta vitoria como parte de la investigación que llevan a cabo para esclarecer estos trescientos setenta y ocho asesinatos de la banda terrorista eta

una parada clave antes de reunirse en madrid con miembros del tribunal supremo y la audiencia nacional aquí en vitoria como capital del territorio donde

y sin embargo el gobierno vasco máximo representante del país vasco no se reunió con el grupo de eurodiputados en vitoria

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez este grupo de trabajo al que usted se refiere no se puso en contacto con el gobierno vasco

que se pusiera en contacto con otras instituciones como este parlamento sede de la voluntad de la ciudadanía vasca se trata de una cuestión no solo de respeto institucional

dice que no han contado con usted que le hubiera gustado que la delegación de eurodiputados desplazada a españa le hubiera llamado se hubiera puesto en contacto con usted

no se comunican entre ustedes usted ya sabía que esta delegación llegaba a vitoria y lo sabía porque su eurodiputada izaskun bilbao era conocedora del hecho

y tampoco envió a ningún representante a esta misión qué curioso

en vox éramos conocedores de este hecho por información directa de nuestro eurodiputado jorge buxadé con quien me reuní y conocí de primera mano todos los detalles

porque además solamente existe una sola respuesta a esto a usted no le interesaba lo más mínimo recibir a esta delegación a la que su partido ya cerró la puerta en europa añadía usted que le hubiera gustado contar las políticas que desarrolla el gobierno vasco en defensa de la memoria de las víctimas lo dijo

qué les hubiera contado el maravilloso instituto gogora y el blanqueamiento de eta que este instituto hace a diario o quizás la nueva ley de memoria histórica vasca esa que ha traído su gobierno a este parlamento y en la que solo se habla de las víctimas del franquismo que ya le adelanto nos parece

e indemnizaciones a las víctimas de eta por ejemplo también ha dicho públicamente que usted es partidario de investigar los cuatrocientos crímenes aún sin resolver porque la memoria debe contemplar la necesidad del esclarecimiento de los hechos qué palabras más emotivas y qué poco significan en este escenario

nada por el contrario han acudido a una manifestación junto a bildu para pedir el acercamiento de presos a euskadi acercamiento de etarras que ni han condenado estos crímenes y ni se les espera y que además no han ayudado a resolver estos asesinatos y que encima se les prepara beneficios penitenciarios así ayudan a las víctimas señor urkullu

a un personaje que defiende abiertamente la extorsión el secuestro y el asesinato como arma política

es dar la cara participar activamente y poner todos los medios a su alcance para poner blanco sobre negro y contribuir a que se haga justicia con las víctimas hay quienes como otegi no se encuentran en el lado de las víctimas y sus familiares sino en el lado de los verdugos

porque usted es el lehendakari de todos los vascos no solo de unos pocos recuérdelo de todos el pasado no se borra ni puede reinventarse y usted
y nuestro pasado el de los vascos por desgracia está escrito con sangre eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez en la anterior sesión de

exageraciones hoy me resulta curioso cómo rehúye usted de su dignidad como parlamentaria vasca ante lo que debería haber sido un gesto de respeto institucional

es difícil entender que no tuviera interés en conocer la opinión del gobierno vasco máxime cuando hemos desarrollado iniciativas concretas en relación con los atentados mortales

señora martínez yo no sé cuándo piensa que hemos nacido los demás ni cuándo ha nacido este parlamento además desde diversas instancias del propio parlamento

a la presidencia de la comisión a que incluyese en la agenda de la visita un encuentro con responsables del gobierno vasco

le aseguro que habríamos estado plenamente dispuestos a aportar nuestra opinión y contribución lo seguimos estando porque este grupo plantea un objetivo que compartimos

a la que se ha hecho referencia en la pregunta anterior el gobierno vasco responde con hechos el cuatro de marzo de dos mil catorce encargamos un informe sobre la situación procesal

fue una iniciativa pionera que ningún gobierno había puesto en marcha con anterioridad este informe se presentó en diciembre de dos mil catorce señora martínez diciembre de dos mil catorce que no es el siglo pasado fue realizado por henar navarro profesora de derecho penal y licenciada en criminología

exdirector de víctimas del terrorismo del ministerio de interior y posterior ministro

el informe fue aportado a las instituciones legislativas ejecutivas judiciales y asociativas para contribuir a preservar los derechos de las víctimas de las conclusiones del informe se deriva que en más del setenta por ciento de los atentados no esclarecidos

y como referencia atemporal señora martínez el despliegue de la ertzaintza se inició a partir de mil novecientos ochenta y dos y culminó en mil novecientos noventa y cinco

de crímenes que en su mayoría fueron perpetrados hace más de cuarenta años en todo caso el gobierno vasco no se resigna y contribuiremos con las iniciativas que planteen este objetivo hemos puesto en marcha el proyecto cuadernos de memoria y reconocimiento

del terrorismo de eta en casos de esclarecimiento incompleto estos cuadernos son una contribución que busca reparar en la medida de lo posible el daño añadido que han padecido estas víctimas su elaboración se basa en un trabajo de investigación documentación y recopilación

el próximo diecisiete de diciembre haremos entrega de medio centenar de cuadernos a las familias de víctimas mortales de eta cuyos casos no han sido suficientemente esclarecidos

y el reconocimiento de estas víctimas nuestra contribución a su derecho a la verdad y a la justicia

además de la verdad disponible a día de hoy un reconocimiento personalizado humano y ético eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

klima aldaketari aurre egitea ardatz atlantikoaren bultzada eta europarekiko integrazioa le recuerdo una vez más cupo o encomienda de gestión

general por lo que el coste corresponde de forma completa al gobierno nunca he entendido su posición siempre negativa y contraria al tren de alta velocidad y entiendo menos

y sin embargo sigan criticando esta obra aquí en euskadi y en cuanto a la encomienda de gestión del gobierno vasco

que se ha demostrado eficaz para agilizar las obras en gipuzkoa en julio del año dos mil diecinueve al finalizar esta encomienda ya planteamos nuestra disposición a darle continuidad

este ofrecimiento planteando la encomienda para la construcción de los accesos soterrados a bilbao y a gasteiz y en cuanto a las soluciones provisionales pactadas debe de quedar claro primero

y segundo cualquier solución provisional será siempre provisional deberá respetar el cumplimiento de los acuerdos y tercero el objetivo es que esta infraestructura se culmine

esencial para la conexión de euskadi con europa esencial

que debemos impulsar sumando fuerzas de los agentes sociales económicos e institucionales para buscar el equilibrio con el corredor mediterráneo es esencial

es esencial para la movilidad interna y la reducción de emisiones de ce o dos

ha sido el último ejemplo de la decidida apuesta por el tren como modo de transporte más verde y más sostenible

sería deseable además que esa mirada fuese acompañada de una condena del asesinato de iñaxio uria así como de todos los sabotajes y amenazas sufridas por las empresas participantes en el proyecto de la y vasca lo cual

eskerrik asko kortajarena andrea mendia andrea zurea da hitza pues el acuerdo sobre el ingreso
mínimo vital cuando ambos gobiernos lo cerremos definitivamente en la comisión mixta de transferencias

vamos a cumplir con un compromiso de este gobierno que es integrar el ingreso mínimo vital en el sistema de garantía de ingresos vasco

compromiso de este parlamento y no va a perturbar la tramitación de la ley porque el anteproyecto que tramitamos en el seno del gobierno

y va a permitir en definitiva finalmente que el gobierno de españa cuente con unos buenos presupuestos eskerrik asko eskerrik asko

esaten que la transferencia va a facilitar los trámites hemos oído hablar de la transferencia de la gestión integral

en decir que no queríamos ser una sucursal de españa edozein kasutan nik gogoratuko dut legebiltzar honen gehiengoak adostutakoa eta

del ingreso mínimo vital y a que se haga de manera integral a fin de reforzar

sino de la transferencia de manera integral que creo que son dos cosas diferentes pero bueno seguiremos atentos a ver lo que da de sí este embrollo baina

una menor efectividad del sistema de garantía de ingresos para sacar a los hogares en situación de riesgo de pobreza de esa situación nos preocupa que el alcance también ahora sea cada vez menor y nos preocupa también que en base a estos datos se hayan hecho ajustes presupuestarios

esta realidad que también está errepikatuko dizut beste behin ere

catorce meses los dos partidos que formamos el gobierno vasco firmamos un acuerdo de gobierno que se comprometía a integrar el ingreso mínimo vital en nuestro sistema de garantía de ingresos

ese objetivo que lo tenemos cerca el pasado mes de septiembre este parlamento con un único voto en contra

el instar a ambos gobiernos a realizar esa transferencia y en eso estamos seguimos trabajando y está cada vez más cerca ese objetivo gracias al acuerdo

aquellos vascos que como ciudadanos españoles tienen derecho al ingreso mínimo vital verán resolver sus trámites en una única ventanilla y con un único procedimiento porque las propuestas de resolución del imv que a día de hoy solo

serán íntegramente gestionadas como con toda transferencia en euskadi analizaremos resolveremos y pagaremos y realizaremos también todos los recursos y no haga trampas en el solitario señora kortajarena porque estamos hablando de legislación básica del estado ustedes están en el congreso de los diputados han participado activamente en la elaboración de esta norma en la ponencia entiendo que

a la convalidación del real decreto votarán afirmativamente a la ley seguramente porque realmente allí no hacen discursos de oposición al ingreso mínimo vital como aquí se escucha con la renta de garantía de ingresos siendo la renta de garantía de ingresos

y me habla usted de personas que quedan fuera del ámbito de la protección de la renta de garantía de ingresos sabe usted y es verdad y esta es la realidad sabe usted

actúa conforme a la ley vigente y la ley vigente es la que tenemos y es la que cumplimos día a día en lanbide cuando llegan los perceptores de la renta de garantía de ingresos a pedirla sabe usted también porque me he reunido con usted y se lo he explicado

contempla muchos más supuestos por eso espero su colaboración activa proactiva en el trabajo de esta ley cuando llegue a esta cámara en tiempo y forma en el trabajo en la ponencia y que alcancemos un acuerdo para permitir llegar a toda esa gente que hoy se nos está quedando fuera por lo tanto

es en ese acuerdo que se ha alcanzado entre el partido nacionalista vasco y el gobierno de españa que lo vamos a materializar a través de la comisión mixta de transferencias y nos va a permitir con la nueva ley en el parlamento aprobada poder atender de manera conjunta los itinerarios de inclusión de aquellas personas que están en riesgo de vulnerabilidad y sobre todo repetir por último este beneficio añadido del acuerdo que es un efecto político fruto de los acuerdos que solo cuando se alcanzan acuerdos se hacen grandes avances políticos

unos presupuestos generales del estado aprobados que ustedes aparentemente también van a aprobar y que no entiendo por qué aquí en euskadi no parece que vayan a tener ese mismo interés en aprobarlos como tienen en el congreso de los diputados siendo
presupuestos perfectamente alineados y congruentes eskerrik asko mendia andrea amaitu zaizu denbora

exactamente desde el once de junio reclamando unas condiciones laborales dignas y es que tras veinte años se han cansado y han dicho basta

de desigualdades laborales por causa de género las trabajadoras del guggenheim están pidiendo la eliminación de la brecha salarial

de sus salarios que son exactamente los mismos que cuando empezaron y muchas de ellas llevan desempeñando esta labor desde que se inauguró el museo

por no hablar de los horarios las cargas de trabajo que son literalmente insostenibles bajas de compañeras que no se cubren y metros y metros cuadrados de museo por limpiar en un tiempo

que no les da y cómo se ha llegado a esta situación pues simple y llanamente

que se acercan con sus currículos a las empresas de subcontratas de trabajo temporal

se topan con una polarización laboral para ellas trabajos altamente feminizados jornadas de trabajo interminables salarios más pequeños en el mejor de los casos en este caso son novecientos euros mientras que para ellos

se les conceden mejores puestos como pueden ser el de cristalero o el de

y ante esta situación cuál fue la respuesta que se encontraron de los representantes del museo y de la empresa adjudicataria primero la amenaza por despido otro clásico

y como tampoco funcionó y como tercera y última opción vacío informativo este verano nos hemos hinchado

y la necesidad que tenía el puppy de cambiarle las flores en todos

y en muy pocos sitios salían las reivindicaciones laborales de estas

por eso después de cinco meses de huelga después de todo este tiempo sin cobrar un sueldo por parte de estas trabajadoras desde mi grupo parlamentario le preguntamos qué acciones está llevando el departamento de trabajo y empleo para desbloquear esta situación

mi departamento como autoridad laboral que es igual que el ministerio de trabajo que dirige su partido actúa

y la legitimidad de la negociación colectiva corresponde a la empresa y a sus representantes y nosotros lo saben tanto los representantes empresariales como los representantes sindicales a disposición de ellos para ser facilitadores de esas soluciones hay algún caso muy reciente conocido en el que hemos sido capaces de dar respuesta a una negociación colectiva complicada y de ofrecer nuestros servicios con éxito para encontrar soluciones acordadas en esta ocasión concreta que se refiere usted en su pregunta oral

para intervenir la última vez que la ofrecimos en este caso en concreto fue el pasado viernes y a día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta gracias

museo con financiación pública en su gran mayoría creo que sí le corresponde a la administración acercarse a solucionar ese problema

que sea recurrente que en todos los museos vascos hay un año sí se dé esta misma situación hace un par de años estuvo el artium tabakalera bellas artes de bilbao

y esto es debido al modelo de gestión que se ha elegido un modelo de gestión precarizador con las condiciones laborales de las personas que

se da cuenta usted de la frustración que tienen que tener estas señoras

anuncios contra la brecha salarial y ven que por parte de su administración no se les acercan si nos

labrechaexiste cuántas de las reclamaciones que hacen estas trabajadoras

se ven reflejadas en esta web falta de sensibilización empresarial segregación sectorial segregación ocupacional

mendia andrea zurea da hitza mire la respuesta completa a la pregunta que usted realiza hoy en esta cámara la tiene usted desde hace un mes

en cualquier caso voy a utilizar la pregunta que utiliza que ha realizado usted hoy para actualizar la información de esa respuesta dada y no ha cambiado demasiado porque la huelga se mantiene

son las que ya hemos explicado la primera que al recibir la comunicación la fundación del museo guggenheim solicitó servicios mínimos y la dirección de trabajo no los consideró oportunos

externos o internos es decir por otras empresas o personas de la misma empresa no ligadas al servicio de limpieza y tampoco nos consta ninguna denuncia sobre un hecho

nuestra disposición a facilitar una solución al conflicto desde el respeto que es lo que debería tener esta cámara desde el respeto a la negociación colectiva

por tanto y como conocerá usted por la respuesta ya facilitada a este parlamento por escrito respeto máximo a la negociación colectiva y disposición máxima también a la búsqueda de soluciones acordadas esas son nuestras acciones

si se refiere a las razones de fondo que puede ser la precariedad laboral con respecto a la precariedad

es que se esté buscando una solución a través de la mesa de diálogo social en el marco del gobierno de españa y del ministerio de trabajo y otros ministerios que participan en ese

salarial en concreto en el sector de la limpieza el pasado mes de febrero reedité e hice llegar a este parlamento un libro el trabajo de igual valor que precisamente analiza las desigualdades y la brecha salarial en el sector de la limpieza pero hace dos semanas también realicé

donde dimos a conocer el primer estudio sobre la igualdad y la brecha en los distintos convenios está disponible en internet para quien quiera leerlo y el próximo veinticuatro

en esta materia así que nuestra prioridad en el departamento es trabajar la igualdad y luchar contra la brecha salarial

apoyamos el liderazgo empresarial de las mujeres y también vamos a trabajar por el protagonismo de las mujeres en el ámbito rural ayudados de los fondos europeos por lo tanto

de la representación sindical y de la representación empresarial y que nosotros estamos dispuestos a facilitar

muchas gracias señora presidenta señorías miembros del gobierno señora garamendi

relativa a la cuestión de medidas que es posible adoptar para prevenir el fraude y la corrupción como se sabe en todas las sociedades avanzadas en todas de esto no está libre ninguna

es una preocupación ciudadana y tiene siempre consecuencias sobre las propias administraciones y la propia percepción que se acaba teniendo del funcionamiento de las instituciones

de los fondos públicos esto es evidente y esto manda un mensaje muy negativo sobre cómo debe funcionar el poder público la propia normativa europea hay una directiva que se aprobó hace algún tiempo relativa a la protección

y de hecho ha establecido una serie de medidas tendentes a que los estados traspongan una serie de regulaciones para proteger a estas personas

como usted bien sabe las personas que trabajan para una organización armonización pública o privada

son a menudo las primeras en tener conocimiento de que se están produciendo ciertas irregularidades además de esto lo que suele suceder es que muchas veces estas personas se ven desincentivadas o desanimadas a denunciar estos posibles

decisiones que adoptan sus jefes sus compañeros etcétera porque tienen miedo a posibles represalias es muy habitual que se tenga conocimiento

y por tanto mejorar el funcionamiento de nuestras administraciones pues finalmente no lo haga estas personas que informan sobre infracciones que son perjudiciales para el interés público se suelen denominar como usted bien sabe los que

la llamada de atención y por ello desempeñan un papel clave un papel muy importante pero como le decía

muchas veces por miedo a posibles represalias que son de muchos tipos nosotros conocemos

en todas las administraciones autonómicas en este contexto se aprueba la famosa directiva de protección de las personas denunciantes como usted sabe las directivas son normas que obligan a establecer unos objetivos y corresponde a los estados miembros en este caso

de españa el gobierno central a adoptar las medidas necesarias para trasponer estas normas efectivamente como usted bien sabe la fecha tope la fecha ya límite para trasponer estas directivas era el diecisiete de diciembre de este mes con lo cual yo creo que el gobierno central va un poco tarde porque todavía que yo sepa

y luego se permite la directiva permite un par de años más para desarrollar ciertas medidas en el caso de las empresas que tengan una cierta cantidad de trabajadores

esencialmente lo que va a hacer es garantizar la confidencialidad de todo el proceso de denuncia proteger a la persona denunciante de represalias y especialmente también a las que trabajan en instituciones públicas garantizando

que todos podemos coincidir en que hay que tener especialmente vigilados está el tema de la contratación pública

sería interesante por cierto pero es probable que esté un poquito por encima incluso del

la protección de los consumidores o los propios procesos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas que hemos visto todos conocemos casos en los que hay veces

yo creo que tenemos herramientas para luchar contra esto decía que una parte muy importante de la legislación que va a haber que transponer de esta directiva señora consejera

diseñar un plan y sobre todo va a tener que realizar importantes modificaciones en temas que afectan incluso a derechos de carácter fundamental va a tener que cambiar cuestiones relativas

legislación básica que evidentemente el gobierno vasco no tiene competencia para ello yo no le voy a pedir que haga eso eso es evidente no no se lo pido en absoluto

que hay cosas que sí que se pueden hacer en nuestro ámbito sin necesidad de esperar más tiempo por otra parte como otras veces se ha hecho y sobre todo porque yo creo que

en que yo creo que no solo es necesario sino que haríamos un gran favor a todos

a veces en forma de leyes la mayoría de las veces sobre esta cuestión a veces incluso creando organismos específicos bueno

este verano me parece que ha sido en junio andalucía es la última que ha aprobado una ley sobre esta cuestión su departamento señora garamendi nos tiene muy ocupados a los parlamentarios como usted sabe con un montón de leyes muchas de ellas

sobre el tema de la que impliquen una auténtica modernización de la administración pero bueno en sus discursos usted siempre dice que está muy comprometida con lo que es la modernización de las administraciones y además acabo de escuchar hace un rato al señor lehendakari pues también muy comprometido y le he escuchado pues comprometido por supuesto con la lucha contra el fraude la corrupción etcétera con lo cual yo entiendo que es un punto importante que su gobierno pues quiere destacar por eso le digo que

lógicamente los parlamentarios estamos analizando leyes que nos han planteado y que algunas como usted bien sabe pues se plantearon hasta hace dos o tres legislaturas pero yo lo que le propongo

leyes que me plantean con escaso éxito tengo que decirlo ojalá usted me puede ayudar con los grupos que sustentan al gobierno porque yo he propuesto medidas como la creación del estatuto de un directivo público

de evaluación de políticas públicas o que los altos cargos tengan que comparecer simplemente antes de ser nombrados del todo en fin con escaso éxito hasta el momento espero que me ayude por eso aprovecho esta ocasión

analizara esta cuestión que no la he visto en el programa legislativo del gobierno

y por eso creo que es particularmente importante seguramente la señora consejera me recordará usted a continuación una serie de mecanismos lo digo porque en otra opinión del gobierno ya lo han puesto por escrito una serie de mecanismos que se dice disponer para la prevención pues del fraude la corrupción

me dirá hombre está la oficina de control económico está el equivalente por ejemplo de los ayuntamientos y entidades locales está el tribunal vasco de cuentas públicas tiene usted señor gordillo el ararteko la agencia de protección de datos

y hombre yo le digo sí efectivamente están algunas habría que reformarlas

el acuerdo pues que fue posible fue el que tuvimos finalmente pero bueno en todo caso yo creo que aquí tenemos un margen de mejora muy importante por eso yo creo que estos mecanismos que seguramente usted hará referencia y si no bueno pues ya le hemos recordado no son suficientes

establecer una serie de mecanismos adicionales que sobre todo hagan una cosa señora consejera que es proteger la confidencialidad del proceso es decir si uno mira y analiza

pues aquí se hace referencia siempre a unas cuestiones muy importantes la protección de la persona denunciante garantizándole la confidencialidad no solo a ella sino también a lo largo de todo el proceso de denuncia y sobre todo una denuncia con plenas garantías

y luego una serie de derechos de esas personas denunciantes incluyendo medidas de protección me volverá usted a insistir que aquí hay cuestiones que tienen que ser reguladas a través de legislación básica

para poder ejercer este tipo de cuestiones y poder regular de verdad un estatuto un estatus mínimo al menos de la persona denunciante yo creo que con eso

de lo que son las administraciones públicas pero por lo menos saldríamos yo creo en esta cuestión del furgón de cola por eso señora consejera con todo interés por mi parte le formulo hoy la siguiente interpelación cuáles son los propósitos de su gobierno en tanto que usted también en secretaria del gobierno

gordillo jauna egun on señor gordillo atendiendo a la literalidad de su iniciativa

en relación con la adopción de medidas para la defensa de las personas denunciantes de casos de fraude y corrupción en el ámbito autonómico como bien indica en la justificación de la iniciativa

concretamente la dos mil diecinueve barra mil novecientos treinta y siete relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del derecho de la unión europea esta directiva ha de ser objeto como bien decía de transposición por parte de los estados miembros antes de fin de año

la primera consideración que quiero compartir con usted es la relativa a la oportunidad de abordar una normativa autonómica en estos momentos

en breve pudieran carecer de lógica o verse superadas a la vista de la regulación que haga el estado en relación con la directiva asimismo

cómo se desarrollarían los hechos si desde determinadas posiciones políticas se impidiera cualquier atisbo de asunción de competencias estatales por parte de este gobierno cosa que por cierto

cuando asistimos a la proliferación de leyes que contribuyen a erosionar el ámbito competencial vasco una vez realizada esta reflexión sobre la oportunidad

dos mil diecinueve barra mil novecientos treinta y siete lo cierto es que no resulta tarea sencilla desgranar el contenido de sus mandatos normativos en realidad

sobre la protección de las personas denunciantes o alertadoras contiene más análisis colaterales

en diversos ámbitos sectoriales y en particular en el ámbito hacendístico además se detiene profusamente

y en la descripción del contexto en el que se encuentra el o la informante de las posibles infracciones por razón de su inserción en los entresijos de las relaciones laborales

no describe ni desarrolla con profundidad qué se pretende en la faceta concreta de protección de las personas que informen sobre presuntas infracciones aun cuando efectivamente estas desempeñan un papel clave ya que a menudo son las primeras conocedoras de amenazas o perjuicios contra el interés público en este sentido

quedan más en el plano teórico quizás prácticamente se circunscriben a la existencia de canales privados e internos de denuncia a la protección y gestión del anonimato que a la existencia de registros y procedimientos de reacción todo ello con un inmenso debate de fondo sobre la no afección a los muchos derechos fundamentales

considero que la auténtica visión de la protección de las personas denunciantes procede más bien de la perspectiva procesal situada en el ámbito de la administración de justicia al tratarse de entrada de unos objetivos más bien situados en este ámbito parece prudente y de sentido común como le decía esperar a la trasposición de la directiva para responder para saber antes de final de dos mil veintiuno del gobierno español hecha esta primera aproximación

traer a colación algunos antecedentes del planteamiento que subyace en su interpelación en el congreso de los diputados se sustanció el debate de una proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción que fue rechazada mayoritariamente el diecisiete de junio de dos mil veinte posteriormente

han presentado una proposición de ley orgánica de medidas de lucha contra la corrupción y para la protección de los alertadores cuya tramitación no ha culminado resulta cuanto menos curioso

no es mi intención poner la atención en el grupo proponente de aquella iniciativa sino manifestar la contrariedad que me suscita

posteriormente de una ley orgánica y ahora se suscite el debate en esta cámara esto es el hecho de que atendiendo al mismo ámbito de actuación

y por las que se interpela a un gobierno autonómico nos evoca un panorama

de competencias de todo un estado autonómico en el debate

los grupos parlamentarios ya mostraron su opinión en torno a la proposición de ley del grupo ciudadanos

en aquel debate se criticó la falta de visión que suponía un abordaje directo por el parlamento prescindiendo de la conveniencia de que fuera una iniciativa gubernamental

entre cuyos contenidos de fondo se encuentran sobre todo como ha dicho el código penal y la legislación procesal de enjuiciamiento criminal también en dicho debate

sobre la cuestión de que no hace falta nada en el ámbito administrativo estricto y si muchísimo en el poder judicial la fiscalía y las policías a su servicio se criticó el olvido del sector privado al que se refiere en el mismo plano de la directiva

se les recordó la reserva de ley orgánica para muchos de los aspectos que pretendía regular

que continúa en el congreso ante este escenario le digo con total sinceridad y un punto de preocupación

me parece ciertamente descontextualizado el planteamiento que subyace en su interpelación la respuesta es sencilla primero deben tener un planteamiento

penales y del poder judicial y luego quizás podremos situarnos en el ámbito vasco con mejor criterio en todo caso sí hay una cuestión fundamental de la que como servidores y servidoras públicas de la ciudadanía vasca no podemos ni debemos abstraernos

además de prevenir y combatir la corrupción era berean gobernantza publiko eta autogobernuko sailburu naizen aldetik nire lehentasunen artean daukat

gracias presidenta la verdad es que la estaba escuchando con mucho interés y digo hombre no parece la misma consejera

del sector público vasco mientras teníamos pendiente la aprobación de la legislación del estatuto básico de la que va a depender la efectividad y la eficacia

a ver qué podemos hacer y tal hombre la legislación del estado en todo caso

sino que los contornos competenciales ya están establecidos tiene usted unas leyes muy interesantes en las que fijarse por ejemplo está la última que es la ley andaluza pero está la de aragón está la de valencia que yo creo

en aragón y en valencia por ejemplo desde que se establecieron unos canales realmente con garantías que eso se puede hacer a nivel autonómico unos canales realmente con unas garantías importantes se han recibido cientos de denuncias que han contribuido a resolver muchas cuestiones aquí hemos tenido hace poco y la semana que viene probablemente hablaremos

a las personas denunciantes en la medida de nuestras posibilidades cuantos más canales mejor pues yo creo que es lo adecuado pero es que no se trata de que este

que establezca el estado es que como usted bien sabe señora garamendi tanto los criterios de la ocde que es en el fondo en los que se basa el desarrollo de esta directiva como vamos

el espacio local en nuestro caso incluso por supuesto en el espacio foral

por eso es que no resulta fácil establecer contorno normativo si quiere ya le ayudo yo me pongo a disposición del equipo jurídico de su departamento para echarle una mano

yo por eso señora garamendi se lo planteo a modo de interpelación porque yo creo que efectivamente como es una cuestión compleja porque puede suscitar complejidad usted ha citado efectivamente el tema de la modificación del código penal que esencialmente será eso algo de la ley de enjuiciamiento criminal yo se lo he planteado

una ley como esta lo ideal es que se plantee en forma de proyecto de ley y por tanto venga

y para que tengamos un proyecto de ley en este parlamento y con todas las garantías hacerlo me dice usted vamos a esperar a ver qué pasa a nivel nacional

nosotros seguiremos planteándolo porque yo creo que no es necesario esperar es decir yo creo que perfectamente se puede adoptar unas disposiciones y luego si efectivamente podemos ir un poco más allá

un inconveniente el que nosotros podamos ir empezando ya los trabajos sobre todo teniendo en cuenta que el proceso legislativo pues dura bastante tiempo

tomar las medidas que estén en nuestra mano cuando se toman las medidas que están en nuestra mano y esto lo tienen demostrado informes de muchas fundaciones por ejemplo la fundación hay derecho

y que lea los informes que hay ahí a propósito de las denuncias y de qué manera las denuncias

o de ciertas empresas han contribuido de manera muy eficiente a establecer unas investigaciones y sobre todo

lo que se está buscando con esto es sobre todo desincentivar posibles comportamientos y de esto señora garamendi es que no se libra nadie el ser humano es tan corrupto como la legislación le permite ser por eso yo creo que es conveniente atajar este problema que es una realidad en todos los ámbitos es que lo contrario

y aprobar las medidas que pueden estar en nuestra mano por eso yo creo que perderíamos una oportunidad muy importante si no aprovechamos para desarrollar ahora mismo además que se está empezando a mover la cuestión relativa a las personas denunciantes regular esta parte del ámbito autonómico

lo que pasa es que claro la directiva habla de derecho de la unión el estado por tanto

a lo mejor conseguimos que vaya un poquito más allá y lo haga también en el ámbito del derecho nacional pero bueno a mí me gustaría que en el ámbito autonómico en el ámbito de euskadi pues también tuviéramos estas garantías que creo

testuingurua kontuan hartu gabe pudiera ser cierto que entre la ciudadanía del estado español exista una preocupación considerable en torno a las prácticas corruptas

en cambio si atendemos a la realidad social de euskadi según el sociómetro vasco tan solo el uno por ciento de las personas encuestadas señalan a la corrupción y al fraude como una de nuestros principales problemas

un dato que se mantiene en los últimos estudios publicados y este dato

con el nivel de confianza que la sociedad vasca muestra en sus instituciones

que solo se ve superado por la universidad tengo el convencimiento de que usted reconoce la profesionalidad y el rigor de estos estudios en todo caso

en doscientos ocho regiones de europa es decir la encuesta más grande jamás realizada para medir las percepciones de calidad del gobierno

el estudio destaca asimismo que hemos ido mejorando de manera constante a pesar del descenso de la media general en el estado este dato tiene un gran valor no solo por el puesto en el ranking sino por los indicadores que lo conforman

la corrupción esto es que no haya abusos del cargo público para beneficio privado y la calidad de los servicios públicos

euskadi goza de una calidad en su gestión y una confianza por parte de la ciudadanía

no es una excusa para quedarnos en el sitio en el que estamos todo lo contrario

pero volviendo de manera más directa al tema objeto de su interpelación y sin perjuicio de lo que ya le he referido sobre la regulación de las personas que informen de posibles infracciones lo cierto es que ya contamos con un entramado jurídico institucional para promover la integridad e impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción

todas las administraciones públicas vascas cuentan con instrumentos de fiscalización

contamos con el tribunal vasco de cuentas públicas recién renovada su regulación

el servicio de registro de personal la comisión de ética pública

los órganos judiciales que integran la jurisdicción penal en euskadi y el ministerio fiscal etcétera

además como le indicaba en mi primera intervención tenemos prevista la elaboración de un proyecto de ley de transparencia que pretende estructurar y reforzar el sistema del que nos hemos dotado haciendo hincapié en la publicidad activa el derecho de acceso y la participación ciudadana espero contar con su ayuda

y hablando de proyectos e infraestructuras que pueden estar ligadas al ámbito medioambiental hablamos de instalaciones de tratamiento de depuración de aguas

tratamiento gestión valorización y eliminación de residuos plantas procesadoras de residuos para su reciclaje y recuperación crematorios y otras que dan respuesta al conjunto de la sociedad vasca y que deben ubicarse en el emplazamiento más idóneo para ello y para eso

ez da mitigaziokoa baina obra da eta obra ingurumen ikuspegitik zaintzekoa ya sé que es complejo aceptar desde lo local proyectos que pueden alterar nuestro entorno

y que en un momento podemos poner en duda si eso es de un interés general o no pero es necesario para un servicio social y para un servicio a la comunidad y en este momento nos permite

y caminar hacia la descarbonización de nuestro territorio en algunas ocasiones se ha producido en el ámbito municipal que se ha opuesto a esa situación

evitar la implantación de una determinada actuación que es insisto buena para el interés general y con esta tendencia podemos encontrarnos en que

ante la necesidad de eliminar residuos provenientes tanto

y también aquí nos podemos encontrar en que no queremos poner en marcha instalaciones de tratamiento de esos residuos pero no nos importa cargarlos en un camión y llevarlos a la comunidad vecina y por tanto nos encontramos otra vez en el mismo concepto

podemos tener y ya estamos avanzando hasta este otro otro concepto que es mucho peor todavía que es lo que los americanos llaman el banana que es

es decir no construir nunca nada en ningún lugar que esté cerca de algo es decir ya llegamos a no toquen ustedes nada y estamos acercándonos desde luego peligrosamente

y sorprende me sorprende muchísimo que nos estemos encontrando en esa situación en un momento en el que tenemos que avanzar y precisamente estábamos hablando con el lehendakari hace

de forma intensa con actuaciones desde luego claras hacia la descarbonización hacia la implementación de la economía circular y hacia la racionalización en la utilización de recursos y en la sostenibilidad del sistema si de verdad estamos pensando en que eso es lo que tenemos que hacer

además lleven la concertación con todos los actores pero también es cierto que

pueda existir una posición en contra de una determinada infraestructura demoremos el debate de tal manera que nos encontremos en una situación casi de colapso y eso nos puede pasar con los residuos en euskadi en este momento si no tomamos las medidas oportunas

orokorreko proiektuak ondo definitzen dira se trata de un mecanismo jurídico por cierto señor

en más de once comunidades del estado español entre ellas tres de las que nos rodean nafarroa portzierto zuen babesa duena

la solución que proponemos ha sido adoptada por multitud de comunidades autónomas y otros lugares y desde luego está funcionando con absoluta normalidad porque

el proceso de declaración de qué es un proyecto de interés general su tramitación las características que tiene ese proyecto quiénes son sus promotores las condiciones las determinaciones que tiene que cumplir y la documentación de trabajo

absolutamente garantista y perfectamente regulado que se ha utilizado

baina benetan bi gai dira oso konkretuak oso ondo aztertzen direnak zentzu horretan y finalmente de verdad no entendemos la desazón política

para establecer esa figura la del interés público superior con todas las garantías y desde luego que es a propuesta de quien esté en el departamento de medio ambiente

el consejo de gobierno con todos los consejeros y consejeras y con el lehendakari al frente quienes debaten y deciden si es así

por tanto de verdad no entendemos dónde puede estar el problema cuando además insisto no es un caso novedoso no se nos ha ocurrido a nosotros y existe esta figura en multitud de comunidades autónomas y si se regula bien y si se trabaja bien desde luego ofrece todas las garantías posibles y ese es nuestro máximo interés eskerrik asko

señora tapia como diría cierta ministra le voy a dar algunos datos gestamp después de recibir un cheque regalo incondicional de su gobierno de ocho millónes cierra simultáneamente una matricería petronor multada por exceso de horas extras y con un erte

anulados consecutivamente en los juzgados aernnova poniendo en marcha

perdón un ere con despidos que se ha demostrado innecesario a la vista del aumento de la producción que va a requerir la incorporación de nuevas personas alestis y aernnova

en los ere poniendo los primeros de la lista a aquellos militantes de los sindicatos que más molestaban declaraciones de la patronal a las que se ha hecho referencia anteriormente

aunque ahora no está que el hecho de que haya emergido una ultraderecha trumpista no les hace a ustedes ser menos derecha liberal

a la ultraderecha el presidente del sindicato patronal alavés dijo que algunos sindicatos realizaban prácticas mafiosas el presidente de confebask

y qué han dicho ustedes ahora ha empezado a hacer un amago de reconocer que puede haber en todos los lados prácticas y declaraciones equivocadas

su gobierno y su partido lo único que han hecho ha sido alinearse sistemáticamente con la patronal haga lo que haga y diga lo que diga el señor urtaran que además de ser alcalde de gasteiz es presidente del conjunto de los ayuntamientos vascos ha dicho ni más ni menos que los sindicatos tensan demasiado la cuerda que generan tensión y que dificultan que seamos atractivos no le

a mí perfectamente y usted misma recientemente ha declarado que la huelga de tubacex ha generado un daño reputacional a nuestro país a mí me viene a la cabeza cuando escuché estas declaraciones aquella canción de paco ibáñez que fue uno de los signos de la transición la mala reputación y supongo que ustedes la conocerán que decía aquello de a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe

tener un pensamiento libre y crítico le generaba a uno mala reputación pues parece que en ciertos entornos

a los que diría al servicio de los cuales usted está de la oligarquía de este país hacer huelgas genera mala reputación

es el uso que ha habido abusivo de los ere y de los erte

empresas y las declaraciones inaceptables que sistemáticamente nos brinda la patronal eta horren aurrean esaten nuen moduan zuek inoiz ez duzue esaten

más altos del estado y las relaciones laborales no son la auténtica ley de la jungla es precisamente por luchas como las que se han desarrollado en tubacex y en otras muchas empresas vascas siempre

siempre con su crítica y siempre con su alineamiento sistemático con la patronal eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea señor casanova como le decía previamente desde luego los conflictos no son

ni desde luego en términos generales benefician a ninguna de las partes y lo ideal es buscar una solución consensuada que genere dinámicas de entendimiento no a corto plazo sino una forma de hacer diferente y lo hemos trabajado siempre desde ese punto de vista en una situación como la

vamos a decir y el momento crítico del covid como administración nos ha tocado trabajar para que

para que los pudiéramos complementar para que se diera desde luego

y desde luego siempre siempre buscando solución a conflictos laborales no tanto solo desde mi departamento sino también a quien le corresponde la autoridad laboral desde el departamento de la consejera mendia siempre hemos buscado que el conflicto entre las dos partes llegará a esa solución que pudiéramos llamar ideal sin conflicto en las calles sino que evidentemente una huelga es absolutamente

respetable no sino que es un derecho por supuesto otra cosa es que se generen otro tipo de conflictos como consecuencia de esa huelga por tanto buscar el consenso siempre ha sido nuestro trabajo y lo decía previamente ella pero en muchas ocasiones la búsqueda de ese consenso no parte únicamente porque nosotros como gobierno hagamos nuestro trabajo sino también porque se solicite y como departamento desde luego serán

las veces que nos hemos reunido pero todas y cada una de las reuniones que han sido solicitadas por sindicatos de empresas e incluso por la cúpula de los sindicatos todas y cada una de ellas han sido

y en consecuencia también hacer de puente en unas ocasiones con la parte directiva lo hemos hecho siempre y lo que me extraña es otra cosa señor

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on sailburua sé que estos días son de una agenda apretada y de poner mucho ingenio para tratar de convencer a los grupos de esta cámara de que

que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos are gehiago kontuan hartzen badugu gobernu honek gizarte murrizketen ereduari jarraitzen diola

del proyecto que mantiene su compromiso de garantizar y mejorar las políticas sociales eta hori dela

nos puede decir qué criterio utiliza para afirmar que estos presupuestos contienen el mayor gasto social de la historia eskerrik asko

eskuragarri dituzten baliabideen hazkundeari buruz me dice cree el consejero que estas afirmaciones son realistas me dice evidentemente

y paso a explicarle algunas cuestiones porque comprendo que este presupuesto quizá requiere aclaraciones

primero el aumento del dinero disponible para políticas públicas adicional asciende a ochocientos ochenta y ocho millónes de euros lo que supone un incremento del siete coma seis por ciento esto se explica porque al incremento del gasto real de seiscientos noventa y cuatro millónes de euros

que este año no se han incluido en el mismo y que se van a dedicar a otras cuestiones además ajenas al covid sí hemos mantenido las cuantías completas del fondo covid en salud y en educación con ciento ochenta y cinco coma cuatro y noventa y cinco coma seis

y la segunda cuestión es decir el porcentaje dedicado a políticas sociales en este presupuesto que efectivamente es cercano a los ocho de cada diez euros como usted ha dicho

y este aumento desde luego este es un gran aumento el que se produce también en la política social lo que ocurre que este porcentaje baja en relación el gasto social

porque se ha producido un aumento del cincuenta por ciento en el ámbito de la inversión y esto en términos relativos es lo que hace bajar el peso del gasto social pero sin embargo

más de cuatrocientos tres millónes de euros más de un cuatro coma cuatro por ciento en relación al año anterior eskerrik asko

oinarri gasto social según la rae es el conjunto de transferencias por cuenta corriente realizadas

y con finalidad redistributiva el gasto social sigue siendo el mayor indicador de cuán importantes son para una sociedad las personas vulnerables las que sufren desigualdad las que no tienen acceso a derechos y servicios las que sufren pobreza o las que sufren exclusión social

tan optimistas son ustedes en relación con el mercado de trabajo de verdad calculan

a esta piedra angular de nuestro esquema de protección social quizás para ahorrar

no cuadra con un recorte en inclusión social de veintiocho millónes o con el recorte en acción social de treinta y cuatro millónes o con el recorte en servicios sociales de más de dos millónes no cuadra con el recorte en las ayudas a familias para la conciliación y la crianza de más de cuatro millónes y no cuadra con su propio

del presupuesto se ha destinado a políticas específicas de igualdad

porque un presupuesto realista con la intención de garantizar y mejorar los servicios sociales como mínimo revertiría el recorte del siete por ciento

un presupuesto realista que pretenda superar la desigualdad de género y garantizar la igualdad de trato para toda la ciudadanía no se conforma con un cero coma cuatro por ciento en políticas de igualdad unos con un compromiso realista de gasto social no da cifras

como uno de los polos de generación de empleo de calidad y de cohesión social a nosotras las declaraciones sobre el gasto social no nos parecen realistas behin eta berriro errepikatzen duzue kontua bera pero por mucho que se repitan muchas veces no se convierten en verdad

jauna zurea da hitza bai eskerrik asko no more bla bla bla efectivamente mire le voy a dar la vuelta y le voy a dar otro tipo de explicaciones también para que vea que las políticas

le voy a poner desde nuestro enfoque que va más allá del producto interior bruto

euskadi señora gonzález se encuentran entre los quince primeros países del mundo

la fundación bbva y el instituto valenciano de investigaciones económicas que tiene en cuenta doce variables relacionadas con el bienestar material la salud y la educación

en la primera posición en lo relativo a la educación más de la mitad de la población

eso nos sitúa en la primera posición dentro del estado y entre las regiones europeas más avanzadas en esta variable en el grupo de treinta a treinta y cuatro años contábamos con una posición destacada también en europa

en dos mil veintidós el gasto sanitario per cápita vuelve a aumentar hasta los mil novecientos ochenta y cuatro euros frente a mil novecientos dos del año pasado

de todo el estado por lo tanto le reitero y le demuestro con cifras el compromiso de este gobierno con las políticas sociales y hago hincapié en nuestra apuesta por la inversión pública

el empleo sin duda otra inmejorable política social que entiendo que usted compartirá conmigo

vamos a dedicar aunque sean breves minutos a hablar de la cuestión

según la memoria de publicidad y comunicación institucional del gobierno vasco su consejería gastó en el año dos mil veinte año de la pandemia como todos recuerdan la modesta cifra

faltan importantes partidas por incluir creo que es obvio que esa cifra

sin embargo en el plan de comunicación institucional y publicidad presentado por su gobierno

y cuando comparamos este plan con el presupuesto que presentaron para dos mil veintiuno nos encontramos con algunos detalles inquietantes vamos a calificarlos así primero la campaña de promoción de la escuela pública vasca que estaba presupuestada con trescientos ochenta mil euros

nos han desaparecido setenta y dos mil euros dos el importe total de las partidas de comunicación institucional publicidad y relaciones públicas presupuesto del dos mil veintiuno presupuesto repito

mientras que la misma suma de las partidas por el mismo concepto pero ahora en el plan de comunicación

que por alguna razón no aparecen en el plan tres el presupuesto que han presentado ustedes para el año dos mil veintidós de este mismo concepto suma un total de cinco millónes

un incremento de más del doble de del año pasado que era de dos millónes setecientos cincuenta y tres mil analizando

dedicada a la sala de formación profesional en los centros de educación secundaria que ha pasado de un presupuesto de trescientos setenta y cuatro mil en dos mil veinte a un presupuesto de tres millónes

para el año dos mil veintidós no es el momento ahora ni el sitio

comunicación institucional publicidad y relaciones públicas de su departamento que nos preocupan todavía más cuando su respuesta a algunos de estos desajustes en la comisión de presupuestos ha sido

preguntas a su departamento por escrito pero debemos tener en cuenta que son partidas destinadas a medios de comunicación

cuyo comportamiento puede verse influido por el volumen de las contrataciones que ustedes realizan

cuál es el criterio que utiliza su consejería para el reparto de los contratos de comunicación institucional publicidad y relaciones públicas entre los diferentes medios de comunicación

eskerrik asko zure galderengatik el criterio utilizado es el establecido por las directrices de la comisión interdepartamental de publicidad del gobierno vasco y en todo caso

de publicidad y comunicación institucional de euskadi en relación a la cuantía prevista para el próximo año dado que no tuve la oportunidad de aclarárselo en la comparecencia de la semana pasada

diciendo que las cifras previstas para comunicación en el proyecto de presupuestos del próximo año no son las referidas por usted y la discrepancia se debe a una asignación diferente de los gastos de funcionamiento ordinario de distintas etapas educativas y programas

de acuerdo con el nuevo sistema europeo de cuentas del detalle de los presupuestos presentados

noventa y cinco ciento tres ciento cuatro ciento diez ciento doce ciento dieciocho y ciento veintisiete del tomo correspondiente al departamento de educación en realidad el gasto correcto a imputar a la partida a la que usted hace referencia es de ochocientos setenta y dos mil euros lo que supone

sobre el ejercicio anterior esto es un incremento muy por debajo menos de la mitad del incremento correspondiente al departamento de educación en su conjunto eskerrik asko bildarratz jauna gil jauna zurea da hitza gracias sí que es verdad que me llama la atención que en su departamento tengan esta costumbre de

es verdaderamente curioso pero mire señor consejero este es un tema muy delicado

escuchar criterios más claros criterios más objetivos porque claro la ley marca criterios pero no los concreta

de control del gobierno que nos corresponden haremos un seguimiento exhaustivo de cada euro

porque para que una democracia funcione correctamente es imprescindible tener medios de comunicación que sean verdaderamente independientes del poder político y eso exige por su parte criterios objetivos públicos y transparentes de reparto de los contratos y subvenciones

no creo que esto sea así por eso seguiremos este tema con más detalle señor consejero porque además de ser honrados debemos de parecerlo gracias

las acciones de difusión del departamento se articulan a través del contrato de planificación y compra de espacios publicitarios

sus características están definidas con claridad y transparencia en el perfil de contratante por una parte contempla los anuncios institucionales para todos los procesos administrativos para dar conocimiento de los mismos a toda la ciudadanía así por ejemplo las convocatorias de ofertas públicas de empleo las aperturas de listas de sustitución de profesionales

etcétera por otra parte contempla las acciones de difusión de la campaña de matriculación de la escuela pública vasca que se dirige también al conjunto de la sociedad y también otras acciones que el departamento pueda considerar interesantes por ejemplo

presentziari lotutako aldagaiak por último indicarle que se ha previsto también un refuerzo de las acciones de difusión del servicio que ofrece el consorcio haurreskolak

y a la promoción del servicio que ofrece el consorcio haurreskolak a la sociedad vasca esta dotación económica da respuesta a la solicitud planteada por la proposición no de ley aprobada por este parlamento

entiendo muchas veces que hay mucha documentación tienen muchos temas y a veces no es fácil y de esta manera también

que está trabajada y que creo que le puede ayudar también a llegar a la misma conclusión a la que hemos llegado a nosotros y que el incremento

al año pasado es de un dos coma dos por ciento muchas gracias

señores consejeros señores parlamentarios mire señora

la caída de nuestras vidas con la inauguración del hospital comarcal del bidasoa era un hospital que nos vendieron hasta con salas de parto y esto

se quedan después de treinta y dos años sin quirófano de urgencias durante dieciocho meses

qué medidas va a tomar su departamento para atender las necesidades de los ciudadanos bidasotarras

egun on creo señora muriel que lo primero que

vamos a realizar esas obras qué necesidad imperiosa hay de hacerlas y seguidamente cómo

vamos a llevar adelante esas obras porque son necesarias si queremos seguir ofreciendo esa asistencia de calidad

preparar las instalaciones del hospital de bidasoa a las necesidades futuras de la población del bidasoa

manteniendo el resto del hospital abierto exige de una planificación muy compleja teniendo en cuenta que no se trata de incomodidades esas dificultades que se dan de compaginar las obras de poder hacerlo garantizando las condiciones de seguridad requeridas en nuestras instalaciones para el resto de procedimientos siempre

no es posible los estudios preliminares que tenemos realizados concluyen que es posible prestar en las instalaciones

prácticamente la totalidad de la actividad quirúrgica prevista en la comarca del bidasoa durante el periodo que dure e indudablemente contando también con la colaboración del hospital donostia

es que no ha informado a la población de las alternativas le ha faltado esa transparencia que los ciudadanos necesitamos esas certezas para saber

cambiada nuestras vidas se prevé que se trasladen las intervenciones al oncológico y los ingresos no sabemos cuáles son las soluciones reales de su departamento hace unas semanas

la asociación de asociaciones de vecinos de irún pedía información nos asegura que no va a empeorar la calidad del servicio para los vecinos del bidasoa

y para las intervenciones programadas saben ustedes las dificultades que se van a enfrentar la población para ir hasta el oncológico

al oncológico se han renovado el resto de quirófanos de la red y no se ha dejado sin quirófano y menos sin un quirófano de urgencias y no criticamos la reforma que sabemos y compartimos con usted que es necesaria

pero lo que criticamos es la manera de gestionar esa reforma y la manera en la que ustedes han informado a la población de cómo se iba a efectuar y las necesidades que había la población está desinformada

certezas y saber qué van a seguir siendo atendidos sin dificultades eskerrik asko larrea andrea sagardui andrea zurea da hitza
eskerrik asko me alegro señora muriel que por lo menos tengamos claro que es necesario acometer esas reformas en el

de bidasoa pero sabe también usted que no todas las instalaciones son iguales pero sí son instalaciones que requieren de unas condiciones muy especiales y que por lo tanto las obras que se realizan en esos entornos son complicados de ahí que además la valoración ha sido técnica de las personas que conocen cuáles son las necesidades y cuáles son las condiciones que garantizan

porque no había forma de encajar un circuito de bloque quirúrgico adecuado y porque la seguridad del resto de la actividad se veía comprometida el inconveniente es que hay que desplazarse a otras instalaciones pero la ciudadanía de la comarca del bidasoa va a tener garantizado todo

entendemos que la atención de cercanía es más cómoda aunque la medida sea temporal

y no es diferente tampoco a la que se da en otros lugares en los que no se pone no se dispone de hospital en el municipio tenemos una red de transporte de transporte sanitario también para facilitar todos aquellos traslados que requieran de un transporte especializado mire además yo he hablado de otro matiz que no sé si hemos alcanzado a ver que es el de la prestación del servicio

del espacio porque el equipo de profesionales que van a prestar

el suyo el del hospital de bidasoa a ese respecto además destacó el trabajo que llevan más de dos años haciendo

por qué se ha llegado a esta decisión y con todo eso es el momento es el momento en el que nos dirigiremos a la ciudadanía le podremos explicar cómo queda finalmente la reorganización de los servicios durante el tiempo que dure

tenemos en consideración la incomodidad que vamos a causar pero sobre todo sobre todo nos preocupa el poder garantizar el mejor cuidado de la salud de ese

gracias señora presidenta consejera consejeras señorías buenos días bien es una cuestión puntual la que nos preocupa en este momento con esta interpelación que incide en las políticas de cooperación al desarrollo además estamos en tiempos de análisis sobre la cooperación al desarrollo hemos visto en los documentos del gobierno determinados informes la inminente la futura

la nueva ley de cooperación al desarrollo o sea que estamos en un marco de esas cuestiones y del análisis y de la reflexión sobre la coherencia de las políticas

algo tan importante como eso por eso no es comprensible desde nuestro punto de vista en estos tiempos

a dictaduras o a medios que las promocionan a través de determinadas organizaciones o determinadas asociaciones también estamos en tiempos de análisis de la memoria histórica y democrática en tiempos de la máxima exigencia con el compromiso con los derechos humanos con la democracia y vemos que seguimos asistiendo vía financiación a ong a dictaduras como la de cuba

de cooperación que se gestionan eso nos parece esencialmente grave nosotros

en relación con las subvenciones a la asociación euskadi cuba

informaba que más de tres millónes de euros durante estos últimos años han sido destinados a esa asociación y en concreto más de medio millón de euros vía asociación euskadi cuba a lo que es un medio propagandista un medio de apoyo a la dictadura castrista y un medio de

a través de ese medio de comunicación ha salido en los medios de comunicación el proyecto cuba información ha sido financiado a través

cuba con dinero público y en ese sentido hemos visto con preocupación que ese medio de comunicación se ha dedicado en algunos aspectos

al parlamento europeo a los diputados del parlamento europeo a determinados partidos políticos a la unión europea ha salpicado también incluso al máximo responsable de la política exterior europea

no digamos nada de los calificativos que ha tenido ese medio de comunicación vuelvo a decir subvencionado y apoyado por una

que recibe dinero de la agencia vasca de cooperación ha utilizado ese medio de comunicación ha utilizado su medio

al jefe del estado español para descalificar a las fuerzas armadas

y a nuestra democracia en definitiva en relación con lo que

está claro que esas subvenciones pues están ahí están ahí y yo creo que hay que ser exigentes

en esa discusión de la coherencia de políticas de desarrollo que lógicamente las estamos viendo

importantísima en lo que es el desarrollo sostenible los objetivos del milenio los objetivos de desarrollo sostenible pero también la coherencia de políticas para el desarrollo democrático

de políticas para el desarrollo de los derechos humanos eso nos parece a nosotros fundamental no tiene sentido apoyar a una dictadura a través de subvenciones a una organización no gubernamental el efecto es el contrario al que se persigue en relación con el desarrollo es todo lo contrario son pasos atrás en la convivencia son pasos atrás en el desarrollo democrático y además

que se instalan en el descrédito a figuras institucionales a españa a instituciones europeas a personas a miembros de instituciones representativas

de desarrollo de cooperación al desarrollo muchas de esas a nosotros nos preocupa

reacciones en este momento pues hay también reacciones incluso jurídicas en relación con la organización no gubernamental a la que me refería yo antes actitudes beligerantes

han hablado de incomprensibles estas subvenciones y sí que nos gustaría saber porque yo creo que en este momento de la reflexión a la que me refería antes esa reflexión en relación con

en relación con las cuestiones y de hacer unas nuevas leyes que sean mejores y que desde luego

la política no la propaganda no el descrédito sino todo lo contrario los programas de apoyo a las personas

lo que pensamos es qué criterios inspiran políticamente al gobierno vasco para conceder subvenciones a través de la agencia vasca de cooperación
a proyectos de cooperación que saltan el régimen dictatorial que gobierna en cuba muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

mahaiburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi con dinero público señor

en estos diez minutos que tengo para poder explicarle cómo funciona la agencia qué es lo que hacemos con qué criterios otorgamos esas puntuaciones y concedemos esas subvenciones para trabajar en el ámbito de los derechos humanos y de la cooperación me gustaría

en esta sede parlamentaria debo reconocerle que usted ha venido manteniendo siempre una actitud constructiva en cuestiones relacionadas con la cooperación o con

responsable y colaborativa en esta y en otras áreas también lo hace así en el consejo de dirección de gogora y permítame señor barrio que le agradezca esa actitud

y evaluar la política de cooperación para el desarrollo del gobierno vasco cooperación para el desarrollo no para otra cosa ese es el instrumento que tenemos para canalizar la solidaridad internacional

del desarrollo humano sostenible y la lucha contra la pobreza y las desigualdades baina herritar kritikoak eta aktiboak izatea ere bultzatzen du guztion

alde en esta transformación es necesaria la participación y acompañamiento de agentes diversos del sur del norte dando especial relevancia a la equidad de género a la sostenibilidad ecológica al enfoque de derechos al fortalecimiento de capacidades participación organización y el vínculo local global

no entran las valoraciones técnicas de la agencia sobre sus proyectos

ayuda a colectivos desfavorecidos al margen de los mayores o menores simpatías políticas con sus regímenes en el caso concreto que nos trae usted hoy aquí las ayudas que la agencia ha concedido a la asociación euskadi cuba se remontan al año dos mil once

procedimientos que anualmente se convocan de acuerdo al presupuesto asignado por la ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi y en concreto

se han aprobado en el marco de las convocatorias de ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo que anualmente gestiona la agencia a esta convocatoria concurren numerosas organizaciones y las ayudas se conceden a aquellas entidades que obtienen mayor puntuación

de los proyectos presentados y todo ello de acuerdo a lo que prevé el decreto regulador de las ayudas y la convocatoria anual correspondiente así entre dos mil once y dos mil veinte la asociación euskadi cuba ha resultado adjudicataria de diez subvenciones en base a diez proyectos por un monto total

zuzendaritza organoetan el tradicional apoyo a estos proyectos no ha generado hasta ahora nunca

y permítame que le detalle los diez proyectos para que vea usted que no hay ninguna cuestión extraña de la que usted hoy ha arrojado en esta sede parlamentaria en el año dos mil veinte

desarrollo agroforestal sostenible una opción para el empoderamiento de la mujer en guantánamo de aumento de capacidades de las mujeres de cuatro cooperativas de producción agroecológica de frutales fortalecimiento de la cadena productiva con la creación de dos fábricas de cajas cinco puntos de venta

en el año diecinueve otro proyecto empoderamiento de las mujeres en el programa de frutales para enfrentar el cambio climático en ecosistemas frágiles de baracoa

de las cooperativas para que lideren la producción comercialización de frutales a través del manejo cuidado de ecosistemas empleando alternativas agroecológicas usando abonos ecológicos biofertilizantes etcétera subvención

otro proyecto subvencionado urbanismo sostenible participativo con empoderamiento de mujeres como alternativa viable para los efectos del cambio climático para fijar las bases de una planificación urbanística resiliente generada desde la participación ciudadana bostehun eta laurogeita sei mila ehun eta laurogeita bederatzi

equitativa y sostenible para el acercamiento a la ciudadanía vasca de las experiencias de solidaridad desarrolladas en y entre los pueblos rescatando el apoyo

e incrementando la producción de materiales originales en euskera y

otro proyecto en el año dos mil diecisiete apoyo a la producción de alimentos

para el fortalecimiento de capacidades en el manejo sostenible de áreas forestales y demás

para el acercamiento a la ciudadanía vasca de las experiencias desarrolladas en y entre los pueblos en equidad justicia social desarrollo sostenible y solidaridad

diagnóstico participativo de género y plan de acción estratégico proequidad para la realización de un diagnóstico de género y la consiguiente elaboración de un plan

en el dos mil catorce apoyo a la producción de alimentos y reforestación en el municipio manuel tames de guantánamo para el fortalecimiento de capacidades en las personas e instituciones vinculadas con el manejo sostenible de las áreas forestales

proyecto cuba información comunicación con perspectiva de género para solidaridad y el desarrollo para el acercamiento a la ciudadanía vasca de las experiencias de equidad justicia social desarrollo sostenible solidaridad

sostenible para la soberanía alimentaria en jiguaní para el incremento de producción de leche y carne rehabilitación de canales de regadío y capacitación técnica doscientos veintidós mil doscientos noventa euros emakumea

empoderamiento de la mujer en el entorno rural mejoras en la producción agrícola ganadera reforestación en definitiva proyectos de transformación social con perspectiva de género todo ello muy alejado de la exaltación del régimen dictatorial que usted menciona ninguna de las ayudas del gobierno vasco

directa o indirectamente ninguna de sus subvenciones se destinan a minar a europa ni al estado español

todo lo contrario y en este caso se trata en todos los casos de proyectos de cooperación al desarrollo de defensa de los derechos humanos

euskadi es uno de los referentes claros de la llamada cooperación descentralizada a nivel internacional tanto por el volumen de fondos como por las políticas e iniciativas desplegadas y goza de un gran reconocimiento y prestigio y en gran parte por esta clara apuesta por los derechos humanos

por este decidido apoyo a los derechos humanos en distintas partes pero no hay propaganda ni hay descrédito simplemente es defensa de los derechos humanos

consejera por su respuesta agradezco la información

interpelación porque yo creo en la cooperación al desarrollo creo en la cooperación al desarrollo creo en la defensa de los derechos humanos en las libertades en el bienestar de la gente y de las personas

que es cooperación al desarrollo subvencionar a través de programas de organizaciones no gubernamentales a medios de comunicación que saltan regímenes que menosprecien además a otros usted me contestaba directamente en la respuesta

que en dos mil diecisiete cuba información en dos mil quince cuba información en dos mil trece cuba información

y eso es lo que le he dicho yo en la primera parte no me quiero extender porque yo creo y yo le aconsejo a usted que pediría que investigaran que lo hiciesen

los títulos de algunos programas de cooperación pues lo pueden aguantar todo cualquier título usted ha leído una serie de títulos de programas y bien y pueden tener un sentido positivo pero igual esconden algo que ustedes no han sido capaces de percibir en relación

supuestos programas de cooperación a mí sí me gustaría una evaluación en relación con esos programas exactamente después de saber que se han visto financiadas

de las arcas públicas por dinero de los fondos de la agencia vasca de cooperación de este gobierno o sea actividades que han tenido esa calidad propagandística y de menosprecio a otras instituciones como le he dicho yo antes

de los directivos de la ong en algún caso es decir que se han enredado en discursos políticos

en debates públicos en relación con la defensa del régimen o sea que yo creo que hay cuestiones cualitativas que hay que analizar que hay que analizar vuelvo a decir en el margen de la coherencia

vinculadas a la exigencia democrática también vinculadas al respeto a los derechos humanos ya debatiremos alguna proposición no de ley en relación con esa cuestión más general

que identifican el problema que yo les he dicho y vuelvo a decir yo le pido que haga un análisis a fondo de estas cuestiones

en los medios de comunicación han sido denunciadas públicamente por personas que se han visto afectadas por esa

con medios públicos y que lo han criticado es decir yo he oído y he visto que una persona tan importante

hacía una reflexión en relación con esta situación es decir

incomprensible y un error mayúsculo que se apoye

un país democrático hubiera hecho lo mismo lo habríamos considerado inaceptable inaceptable hubiese sido inaceptable sigue siendo

haya financiación a medios de comunicación que descalifiquen a instituciones europeas o españolas

exalten los valores del régimen castrista que son los contrarios a la democracia

yo desde luego le agradezco la información en relación con la política de cooperación yo comparto con el señor ortega reflexiones sobre cooperación y estamos muy cerca en relación

en el futuro las líneas de actuación en lo que pueda ser la futura ley los futuros planes en relación con la cooperación pero hay cuestiones que a veces se escapan de algún tipo de control y tenemos que ser muy exigentes en muchas cuestiones que tienen que ver con la transparencia con la coherencia de políticas

verdaderamente a las personas necesitadas y no se pierdan en operaciones de marketing operaciones

eskerrik asko mahaiburu andrea yo respeto todas las opiniones de todas las personas pero como usted habrá comprobado la información que le he trasladado en mi pequeña intervención

respondiendo a las necesidades y retos de la población local en el desarrollo rural en la alimentación en el cambio climático el empoderamiento de las mujeres

proequidad de género y tres de ellos fueron proyectos de socialización de la información para el acercamiento a la ciudadanía vasca de experiencias de solidaridad

entre los años dos mil trece dos mil quince y dos mil diecisiete es decir hace ya más de cuatro años que no entiendo ahora cuál es la polémica que quieren

es baremación que se hace desde un punto de vista técnico es una otorgación en función de la mayor puntuación y es una resolución y después posteriormente se hace un análisis

que se han presentado para luego poder financiar la totalidad del proyecto usted sabe que primero se da una cuantía

entonces yo de verdad lo único que sí que le puedo decir es que siempre va a encontrar este gobierno a este departamento y a esta consejera en la defensa radical de todos los derechos humanos de la libertad y de la democracia

ni hemos exaltado ninguna dictadura faltaría más o sea es que

de cooperación y que además estamos ya trabajando y usted sabe cómo lo estamos haciendo de una forma participativa creo que en el ámbito internacional la propia doctrina dice ya que tenemos que avanzar en esa coherencia de políticas para el desarrollo se han producido importantes cambios en el escenario internacional y los problemas que atañen a los procesos de desarrollo plantean nuevos desafíos y creo que

esas leyes que tenemos esos programas y esos procesos para cumplir con todo lo que hemos venido realizando durante décadas

la justicia social o la sostenibilidad requieren de una perspectiva que va mucho más allá

así como de procesos de colaboración de acompañamiento que requieren financiación pero también intercambio de experiencias

la coherencia de políticas para el desarrollo plantea un nuevo horizonte de trabajo que vincula la política de cooperación con otras políticas tanto

como en otra serie de cuestiones teniendo en cuenta diversos actores

y ello pone sobre la mesa nuevos desafíos para esa cooperación que debe encontrar su propio hueco su papel su contribución específica en el avance de la agenda puede estar seguro que nuestra cooperación vasca entre otros objetivos seguirá trabajando por los derechos humanos y promoviendo sociedades libres y democráticas señor barrio estoy convencida que en estos objetivos coincidimos

y estoy segura que desde ese consenso y ese respeto a la pluralidad usted y yo vamos a seguir apoyando causas comunes como los pueblos saharaui venezolano colombiano

más allá de las características de sus gobiernos que nada tiene que ver el pueblo con el gobierno y como le he dicho las ayudas que concedemos

y ninguna subvención se destina a minar ningún gobierno son subvenciones destinadas

coincidencia plena señora etxebarrieta yo creo que además la inmensa mayoría de esta cámara reconoce la violencia hacia las mujeres reconoce la violencia machista y por ello yo espero y deseo que en este trabajo que estamos realizando de una forma intensa de cara a aprobar esa ley

sabemos que nos enfrentamos a un problema que es complejo y que requiere de una respuesta integral y coordinada euskadin emakumeak hiltzen jarraitzen duten bitartean ezer ez da nahikoa

saiatzen gara y si me permite la expresión mientras siga habiendo

es permanente en el tiempo y tratamos de actuar sobre el origen de la violencia

y trabajamos en diferentes planos uno desde la prevención

futura sociedad sin violencia que queremos construir y por otro lado en el más corto en el más urgente a través de la atención de la protección de las mujeres que están sufriendo ahora mismo las consecuencias de la violencia y lo hacemos con la vista puesta en objetivos que están recogidos ya en el séptimo plan de igualdad que es nuestra hoja de ruta para dar respuesta a una vulneración de estos derechos

con la judicatura con la fiscalía y con otros agentes implicados en el marco de esa comisión del segundo acuerdo para la mejora en la atención a las mujeres víctimas y por tanto lo hacemos con esa visión amplia de país

creemos que es necesario mantener potenciar

además de coordinar en el marco de la comisión del segundo acuerdo de servicios forales municipales desde el gobierno vasco tenemos nuestros esfuerzos puestos en recursos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

el servicio especializado de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia novecientos ochocientos cuarenta ciento once la gestión de la ayuda económica de pago único para mujeres el servicio de asesoramiento y formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas

el programa de acompañamiento zurekin el centro coordinador de violencia contra las mujeres asistencia jurídica gratuita

de ese procedimiento de actuación ante situaciones de violencia de género y agresiones sexuales sección de vigilancia de género de la ertzaintza implantación progresiva del proyecto eba un sistema digital de gestión compartida de todos los expedientes por delitos de violencia de género y de policías locales

grupo policial especializado en trata de mujeres y niñas renovación del material audiovisual que se muestra en las ertzainetxeas a las víctimas con una mirada interseccional

becas educativas para estas personas traslados de expedientes académicos implementación del segundo plan de coeducación

medidas de acción positiva para las mujeres en situación de violencia de género en la renta de garantía de ingresos servicio de mediación laboral de lanbide con al menos una persona tutora para mujeres víctimas en cada una de sus cuarenta y dos oficinas con asesoramiento para la realización de su plan de inserción sociolaboral baremación adicional

y asignación directa de viviendas en régimen de alquiler en casos graves y excepcionales entre otras muchas y nos pregunta qué estamos haciendo para mejorar esta amplia red de recursos bueno podemos decir que estamos avanzando en tres aspectos fundamentales que derivan directamente

duros es necesario adaptarse a las nuevas realidades y para eso

esa reflexión y los tres aspectos en los que creemos que tenemos que incidir y que estamos trabajando para ampliar la red de recursos son el refuerzo de la coordinación como no puede ser de otra forma el impulso de la formación de los profesionales que atienden a mujeres víctimas

y el fomento de la investigación que es aquí donde su preocupación por el análisis que tenemos que hacer de cara a ver cuál es la realidad encajaría perfectamente yo creo que son tres aspectos fundamentales a los que hay que añadir otras serie de mensajes o de enfoques que tienen que ver con la interseccionalidad a la hora de atender a las víctimas o el impulso del empoderamiento

de los muchos pasos dados tenemos todavía ingentes desafíos por delante nos mueve la mejora continua nos encontramos en un momento clave en el trabajo para reforzar las políticas de igualdad

de aprobar esta ley con un amplio consenso que nos permita seguir avanzando como ustedes saben

tiene que ver con el refuerzo de los recursos económicos humanos y técnicos para el desarrollo de políticas de igualdad y de prevención también tiene que ver con el refuerzo del enfoque de género y de los derechos humanos en favor de la igualdad en todos los ámbitos de intervención frente a la violencia machista contra las mujeres

es facilitar la implementación o implantación generalizada en todo el sector público institucional vasco

subvenciones incluso también y contratación pública y el impulso de la formación en igualdad del personal de la administración que como le decía creemos que es una parte fundamental para seguir construyendo una euskadi en igualdad hay que trabajar en la coeducación en las aulas hay que poner

a la violencia machista tenemos que ir sembrando desde

hacen desigualdad una considerable ampliación del sistema de atención a las víctimas de todas formas de violencia contra las mujeres eso también está incluido en esta modificación de ley una detección de los sistemas de detección temprana hablábamos esta mañana en barnahus también cuando hablábamos de los abusos sexuales a los niños

en estas materias y un reconocimiento al derecho a la reparación de las víctimas

lo que está pasando para poder acertar en las políticas que implementemos y luego también una profundización en la sensibilización ciudadana tenemos que seguir sensibilizando tenemos que seguir trasladando estos mensajes que es

situaciones de desigualdad o de violencia contra las mujeres por el hecho

por tanto hay que trabajar de una forma importante en el empoderamiento de nosotras de las mujeres y

ekarriko dituen hobetzeko aukerak aitortzea y en este marco encaramos también el reto de firmar el tercer acuerdo para la mejora de la atención a las mujeres víctimas

lo hagamos en este marco y de manera coordinada con el resto de instituciones iremos dando pasos en esos nuevos desafíos porque queremos que esta modificación de la ley se

por la igualdad y por la erradicación de la violencia contra las mujeres y como siempre décimos lo vamos a hacer en equipo porque no hay otra manera de hacerlo y todas y todos

lo merecen las mujeres que sufren esta violencia y creo que también lo merecen sus hijos e hijas eskerrik asko eskerrik asko artolazabal andrea etxebarrieta andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea estoy de acuerdo con usted señora etxebarrieta que tan importante es el qué como el cómo

soy una firme defensora a veces es mejor hacer las cosas de una forma compartida contando con aportaciones

para conseguir un objetivo amplio con un consenso amplio que hacerlo de una forma impositiva y sin contar con la opinión

esa capacidad de escuchar y de aprender que usted me solicitaba

implementado en todas las cuestiones importantes y relevantes que este país

y creo que va a ser en esta materia en concreto todavía más necesario que nunca si cabe no nos cansaremos de repetir que es necesario fomentar esa coordinación entre las instituciones para poder llevar adelante esas políticas de atención a las mujeres víctimas que yo creo que además llevamos una trayectoria importante en euskadi con más de veinte años desde la firma de un acuerdo para mejorar

hablamos de ese carácter participativo yo creo que la ley ha sido un ejemplo de esa participación más de cuatrocientos aportaciones tanto de la sociedad civil

de consenso de un consenso social a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres y creo que ese consenso cada vez es mayor

generosos a la hora de llegar a esos acuerdos nos demanda más acciones y nos demanda que nos escuchemos y que les escuchemos con atención y estamos hablando de esa comunicación fluida que mantenemos desde el gobierno con las víctimas de violencia escuchando sus demandas comprendiendo sus actuaciones yo me he reunido personalmente

me expliquen directamente cuáles son sus sensaciones en qué estamos fallando qué es lo que necesitan

eso es lo que tenemos que ir siguiendo

todos los agentes y todos los responsables en esta cuestión

y desde su posición porque tenemos que avanzar en equipo hablamos de ese trabajo que lo llevan adelante centenares de agentes sociales económicos políticos

hablamos de ese trabajo colaborativo yo creo que en ese trabajo colaborativo ya hemos llevado a cabo cuestiones importantes en ese proceso de reflexión colectiva para la mejora del sistema de atención a mujeres y a niñas que sufren la violencia

esa investigación que le comentaba en el primer turno de intervención entrará ese análisis que a usted le preocupa y que a nosotros también nos

es un problema que tiene que ser adoptado desde una forma transversal con aportaciones de cada grupo para poder mejorar

y yo creo que tenemos el mismo objetivo tenemos que modificar una ley tenemos que hacerlo cuanto antes para que esas medidas que están incorporadas en esa ley beneficien

que consigamos ese consenso porque en su mano está el que podamos en la mano de esta cámara está el que podamos mejorar esos recursos esos programas

y que la aprobación de esa ley va a permitir dar esas herramientas nuevas para seguir luchando y avanzando en igualdad en euskadi porque

está en juego el derecho de las víctimas de las mujeres de los hijos

a que sea una sociedad realmente igualitaria y esto creo que nos tiene que

de trabajar en equipo y creo que tenemos una oportunidad para demostrarlo eskerrik asko eskerrik asko